presidente andrea yo no voy a repetir exactamente

el propio partido popular que son reflejo de alguna rueda de prensa ofrecida en concreto por parte de los socialistas el doce de marzo de este año

ofrecida el dieciocho diecinueve de agosto por parte del señor maneiro lo que sí me llama bastante la atención es que en aquella rueda de prensa el partido socialista con la señora mendia y el señor unzalu

no se sentían competentes decían le corresponde al pnv decidir el cese y a nosotros no nos compete

upyd iba a pedir la dimisión de la directora general de e i te be ustedes

y son una auténtica comparsa política de upyd lo mismo que el partido popular sorprendentemente en efecto se descuelgan con la petición de la dimisión

desde el pnv queremos reiterar que para nosotros e i te be constituye uno de los pilares fundamentales del autogobierno vasco y le pedimos que prosiga

impulsando al mismo tiempo la cultura vasca y el euskera eitb euskal autogobernuaren funtsezko zutabe bat da eta eskatzen diogu

pluraltasunez baita ere bizi dugun egoera zail honetan así pues desde el pnv queremos expresar y reiterar de manera explícita nuestro apoyo a la dirección actual de e i te be y a sus profesionales

porque están desarrollando una labor más que buena positiva así como plural en unos momentos de claras dificultades económicas y también del propio mercado audiovisual señorías aquí no vale una carrera para ver

más gorda más burda más sectaria y manipuladora en contra de e i te be aquí no vale la telebasura política para tratar de convertir en un campo de batalla en una institución para el pimpampum sin base ni razonamiento alguno no todo vale señorías y no son aceptables generalidades o críticas manipuladoras de brocha gorda

de upyd y en parte del partido popular nos podemos esperar de todo ahora

nos sorprende o igual no tratándose como estamos tratando de e i te be sus críticas no son objetivamente justas ni están justificadas

mínimamente sólido les pido que no conviertan a e i te be en un chivo expiatorio de sus propios problemas electorales o de otro tipo e i te be de manera profesional lo único que hace es reflejar la realidad y sus diversas situaciones al servicio de los ciudadanos

a pesar de ser un recurso fácil y facilón una tentación fácil y facilona y respeten a los profesionales de e i te be e i te be no tiene la culpa de sus problemas el control y las críticas no son solo

no en vano se trata de un grupo multimedia de carácter público pero

caer en la exageración en proferir exabruptos y hacer seguidismo de otros les descalifica a ustedes mismos no hagan telebasura política por favor voy a tratar de responder y de razonar

escorados a los nacionalistas yo ya les dije que las relaciones entre los partidos o poderes públicos y los informadores siempre históricamente desde antes de que guttenberg inventara la imprenta han sido realmente tenemos que tener en cuenta el papel y la posición de cada uno en el proceso comunicativo a los partidos políticos siempre nos puede parecer que lo que décimos y lo que hacemos

al pnv también le puede parecer eso mismo y en muchas ocasiones podemos pensar que tampoco nos han sacado lo necesario ni tampoco el corte más adecuado sin embargo todos debemos reconocer que tenemos una perspectiva limitada y legítimamente partidista

pero es partidista cuando los profesionales de la información tienen necesariamente una visión más amplia y de conjunto de la realidad de cada día que la deben observar y tratar de manera profesional y no partidista velando por el interés y al servicio de una ciudadanía democráticamente madura e informada hablan del sociómetro vasco yo niego la mayor

la sanidad la educación la cultura pero la agenda informativa la actualidad informativa es cambiante y evoluciona y nosotros estamos metidos en un círculo vicioso

reconozcamos que los partidos políticos también marcamos buena parte de la agenda informativa y de actualidad somos prescriptores en ese sentido dependiendo en muchas ocasiones de nuestra capacidad de generar noticias en lo que influye enormemente si estamos

o no en consecuencia los medios de comunicación se hacen eco de nuestras declaraciones decisiones y actuaciones pero eso sí si no lo hacen entonces nos quejamos eso es un circulo vicioso

seamos serios es que no hablamos continuamente por ejemplo del derecho a decidir o del conflicto vasco sí de cataluña o de escocia sí

de los presos y de las víctimas sí también de la crisis económica de la industria del paro

del turismo de la sanidad de la educación del medio ambiente sí y así lo reflejan los medios pero los asuntos más puramente políticos de esos también hablamos por tanto no nos quejemos de que los medios de comunicación incluida e i te be

esos temas no responsabilicemos a los medios y en particular a e i te be de nuestras propias decisiones y responsabilidades y les aseguro que si analizamos objetivamente las agendas informativas de los distintos medios de comunicación que nos circundan no difieren en nada de la que aborda también seamos serios y justos señorías y no nos dejemos llevar por partidismos ni por sensaciones o impresiones no sustentadas en datos razonados y objetivos no hagamos amarillismo político se habla de la audiencias bueno no me va a dar tiempo

prácticamente un treinta por ciento en los últimos años y en estos momentos nos encontramos en el mismo nivel

con el mismo nivel de unos ejemplos miren isabel

reportajes periodísticos en las cadenas generalistas a nivel del estado cien mil te uve tres ciento sesenta mil euros cada programa por hora en prime time

la transición ese programa de la época del señor surio

hoy en día e i te be para sus dos cadenas cuenta en cada una con euros es decir la mitad hablaba del coste y alguna ha hablado y el señor unzalu también quiere recuperar usted la idea

una idea desmentida por el propio señor surio posteriormente cómo se atreven los socialistas a calificar de escandalosas algunas audiencias cómo descalificarían entonces las audiencias de la época del señor surio vamos a ver hay que tener

vamos a ver al inicio de la época del señor surio e te be dos tenía una cuota del catorce coma siete en el año dos mil nueve

cinco coma dos puntos menos un cuarenta por ciento menos de e te be uno no hablemos

datos de audiencia en determinados meses que es uno de los sustentos para pedir la dimisión

vamos a ver en junio del año dos mil diez e te be dos un ocho coma ocho pero si vamos por ejemplo al dos mil once en junio un siete coma siete en todo el mes en julio

pero qué me está contando por qué no pidieron ustedes la dimisión del señor surio bueno apenas me queda tiempo tengo evidentemente ganas de hablar

de la contribución de e i te be a la convivencia en este país el pasado treinta y uno de octubre firmó como habíamos anunciado un acuerdo con la secretaría de paz y convivencia del gobierno vasco también lógicamente les quiero hablar

y de las posibles irregularidades pero yo sigo diciendo y manifiesto que el pnv seguimos considerando que no existen razones mínimamente objetivas y razonables para pedir esta dimisión

e i te be no es culpable de sus posibles problemas o situación no utilicen a e i te be como chivo expiatorio político partidista no maten al mensajero

pero con argumentos razonados y razonables no aceptamos su campaña de acoso y derribo contra e i te be y su dirección eskerrik asko

ez zirela por cierto señores y señoras del partido socialista pedir la dimisión en estos momentos implica renunciar a cargos públicos o a cargos obtenidos a cambio del voto favorable que le disteis en su día implica eso también

al doce de octubre han ocurrido muchas cosas sobre todo que no se ha enderezado la línea que se estaba llevando sino que se ha profundizado y señor uribe etxebarria

exageración es la caída de la audiencia exageración es tener seis horas y media

de e te be uno eso son exageraciones señor

no están cumpliendo con los acuerdos de marzo de dos mil trece eso es lo que está ocurriendo

dimitiría ahora mismo porque se constata que no tiene los apoyos necesarios para continuar con su labor y segundo porque quienes dicen defenderla lo hacen de una manera vergonzante y ustedes señores del pnv

una enmienda en la que trasladaban la responsabilidad

a e i te be para que prosiguiera para que prosiguiera con su labor ustedes no defendieron directamente en la enmienda

trasladaron la responsabilidad al conjunto a un ente impersonal no defendieron a la persona y usted hoy aquí se nos ha liado en cifras en números pero no ha defendido la gestión porque no tiene argumentos para defenderla señor uribe etxebarria argumentos y eso es lo que está ocurriendo porque usted lo que ha hecho aquí hoy es retórica pura y simple retórica en cualquier caso señor urruzuno nosotros

acordamos que se cumpliera la ley y teníamos un proyecto que era ese que se cumpliera la ley por el ente radio televisión público vasca lo que ocurre

de cosas que no tienen que ver con lo que estábamos y esto para nosotros es muy sospechoso y por qué le digo que es sospechoso porque qué es lo que pasa que la aceptación de una ope desastrosa que está recibiendo

el más absoluto rechazo de los trabajadores de eusko irratia tiene su contraprestación en la línea editorial qué ha ocurrido para que ustedes hayan cambiado el sentido de su voto

al respecto de los presupuestos de e i te be cuando venían votando en contra este año ustedes se han abstenido han cambiado el voto eso para mí es sospechoso

que ahora eh bildu se mantiene al margen de lo que está ocurriendo en etb que solo se implican en el recorte de los empleos públicos ese es el reparto de cargos

nosotros hemos defendido nuestro modelo hagan ustedes lo mismo usted tampoco ha defendido aquí ningún modelo ha hecho críticas al existente nosotros hemos defendido que se cumpla la ley ese es nuestro modelo

en eso si estuviesemos de acuerdo en que la actual dirección no cumple con eso que no está gestionando un servicio público con las características de pluralidad objetividad y competencia que se le deben de exigir entonces podríamos partir a hablar del modelo pero para eso lo primero que hay que hacer es censurar lo actual

y como nosotros décimos que la propuesta que venga aquí con un modelo que pueda sentirse reflejada la mayoría de los vascos y de las vascas eso es lo que nosotros pretendemos y no es baladí que exijamos eso no es baladí que exijamos la presentación de un programa para la elección que pueda ser candidato o candidata a la dirección de e i te be porque ustedes

hay en e i te be ustedes con su actitud van a apuntalar lo que hay en e i te be ustedes señor urruzuno si hoy no censuran y piden la dimisión de la señora iturbe estarán ayudando a enterrar a e i te be como servicio público

nos alegra que el partido popular y el partido socialista se hayan sumado finalmente a la iniciativa planteada por upyd nos alegra que otra vez

cuesta moverlos nos alegra por lo tanto que efectivamente se hayan sumado al carro de upyd el portavoz del grupo nacionalista nos alegra que nuestra posición haya servido para mover su posición decía el señor

apoya a la señora iturbe y que apoya a e i te be y que el grupo nacionalista apoya a la señora iturbe y que apoya a e i te be es lógico es normal es su radio y su televisión es decir la señora iturbe

le apoya también a usted apoya también a su gobierno al gobierno del partido nacionalista vasco con lo cual es razonable es lógico

que usted defienda lo que ha hecho hasta ahora e i te be porque e i te be es un instrumento a su servicio eso sí pagado con el dinero de todos los ciudadanos por lo tanto no hay sorpresas pero sí le digo uribe etxebarria que nosotros no estamos reclamando de e i te be nada especial para upyd estamos defendiendo que defienda

de los ciudadanos nosotros no queremos nada concreto para upyd no es una posición partidista estamos reclamando que cumpla sus funciones y que deje de ser un instrumento al servicio del nacionalismo hemos puesto muchísimos ejemplos

ni la más mínima autocrítica pero nosotros sin insultar a nadie hemos explicado las razones perfectamente argumentadas

inmediata de la señora iturbe no estamos dispuestos en definitiva que con el dinero de todos e i te be sea un instrumento a su servicio

el partido nacionalista vasco se ha financiado bien durante las últimas décadas ha estado bien financiado el partido nacionalista vasco tiene

paguen con su dinero si quieren a un medio de comunicación para que defienda sus propios intereses pero nosotros no estamos dispuestos a que con el dinero sigamos manteniendo a una dirección y a una e i te be que no tiene otro objetivo más que defender los ideales del nacionalismo no estamos en absoluto de acuerdo

de la directora general de e i te be hacen falta cambios muy profundos no hace demasiados meses nosotros presentamos una iniciativa parlamentaria

del director o de la directora general de e i te be de tal forma que se garantizara su independencia y que la ocupación de dicho puesto pudiera estar basada en el mérito

misma idea para garantizar la independencia del ente público y todos los grupos parlamentarios de la cámara votaron en contra porque todos aspiran a que

e i te be a su servicio y nosotros no queremos en absoluto eso queremos que e i te be sirva al conjunto de la ciudadanía y cumpla las funciones que le marca

hay miles de ciudadanos que en los últimos tiempos ya han dejado de ver y escuchar e i te be que tienen apagado que lo tienen desintonizado que no quieren saber absolutamente nada y esto ha ido en aumento en el último año y medio esta es una realidad

de e i te be eso sí que es telebasura eso sí que es

se dedican a insultar y llamar fascistas a representantes políticos perfectamente democráticos de manera gratuita y con la sonrisa

eso sí que es telebasura eso sí que no haya ningún tertuliano que ose criticar al partido nacionalista vasco sus días en la cadena estarán contados

y siempre en clara minoría en definitiva la dimisión de iturbe es urgente e indispensable

creo que el grupo socialista debe tomar nota y reflexionar y explicar muchas

corresponsables de que e i te be sea lo que hoy es primero

no hicieron prácticamente nada para impulsar el cambio necesario

apoyó a la señora iturbe y lo hizo además sin conocer su programa y ustedes tienen que explicar a cambio de qué apoyaron a las señora

aclarado por qué ustedes apoyaron a la señora iturbe sin conocer su programa qué cambio de cromos hubo es también por lo tanto su responsabilidad termino la señora está inhabilitada para seguir en su puesto en nuestra opinión deben cambiarse muchísimas cosas pero ya mismo lo que tiene que producirse es la dimisión de esta directora general de e i te be por sectaria y por estar al servicio

gracias señora presidenta con relación a otros grupos

aunque tendría motivos para criticar en este tema también al partido socialista hoy

con usted señor maneiro pues qué quiere que le diga para usted la perra gorda como decía mi abuela

si usted quiere aquí arrogarse los méritos de que un único que de verdad como decía mi abuela que para usted la perra gorda podremos o los ciudadanos podrán ver cómo hemos actuado cada uno cuáles son las decisiones que hemos tomado y en función de eso decidirán

si somos comparsas si de nosotros todo se puede esperar o si somos otra cosa a usted señor uribe etxebarria le ha traicionado el subconsciente en algunas ocasiones

ha hablado de la llamada ope claro justamente

la llamada ope porque es que no era una ope es un ere encubierto el partido popular sí que ha dicho eso desde el minuto uno

porque como no se le puede preguntar a la directora porque le hemos preguntado y en el consejo no contestó

la comparecencia de la consejera para que nos explique esas irregularidades que ha habido en el proceso y que han sido denunciados por los aspirantes y también le ha traicionado

sí claro claro que damos temas como cataluña como escocia

claro vamos como si lo hiciera una vez cada veinte años y están todos los días y a todas horas y luego ha puesto le ha traicionado el subconsciente porque ha puesto en el mismo saco y presos y víctimas

por qué el tratamiento que da la televisión es fruto

de la equidistancia permanente y hayque recordar y lo he dicho yo en mi primera intervención sin el plan estratégico

a regañadientes y forzado y luego hay conceptos que usted

pero no sé usted habla de pluralidad de ser serios de ser justos y de imparcialidad pues oiga la pluralidad ustedes deben entender la pluralidad de los nacionalistas y la confunden con la pluralidad de la sociedad vasca pero ahí nacionalistas hay

sacan al gobierno sacan al pnv pero también sacan a bildu

de toda la sociedad vasca no el concepto de imparcialidad hombre

simultaneó la dirección de e i te be pues claro también el concepto de imparcialidad es un concepto raro y luego ya

pero usted ha visto alguno de los debates en el que siempre se insulta a los mismos siempre se va contra los mismos

a determinados contertulios y los moderadores los moderadores no les ponen coto no es que les jalean es que les jalean verdad que sí eso

es imparcialidad eso no es amarillismo político de verdad

ya le digo los conceptos hágaselos mirar de verdad que los entendemos de forma muy diferente se lo he puesto antes el ejemplo usted cree que a una persona que se ha caracterizado

dijo creo que no es de recibo haber venido aquí a someterme a un interrogatorio porque fue un interrogatoria en toda regla será que como él los hace a los detenidos verdad dijeron pues mira para que usted sienta

y en cambio llega un preso de eta que no se arrepiente y hace gala de no arrepentirse

eso sí carta blanca eso es imparcialidad eso es imparcialidad cuando se habla

eso sí hay cuatro que no pagan un duro hay cuatro que no pagan un duro solo somos tres territorios los que

y parte de los que pagamos esa televisión no nos vemos representados en absoluto en esa televisión en absoluto y eso claro yo estoy de acuerdo con algunas cosas que se han dicho aquí y lo dije claro que no es

claro que no se soluciona solo con cambiar un nombre para nada para nada

va a reconducir que no va a hacer de etb lo que la ley le exige que sea etb no lo va a hacer

fue uma más del grupo nacionalista porque causaba sonrojo ver ese debate sonrojo ver ese debate entonces yo creo que lo que tenemos que conseguir entre todos y es

consiga que etb sea un servicio de calidad objetivo

decirles que se están cumpliendo las previsiones de la dirección de e i te be recuerden el cuadro de mando

transparencia y haciendo un análisis muy riguroso y realista del mercado audiovisual teniendo en cuenta restricciones presupuestarias y he hablado de datos y he dado razones señor unzalu y no los voy a repetir porque a penas

lo que intento reiterar es que en relación a las audiencias dispone de unas posibilidades presupuestarias e i te be muy reducidas en relación a otras cadenas y además por su carácter de servicio público tiene unos límites claros y unos valores claros que no puede traspasar cuáles son los programas y que el otro día vino

está alguien en disposición de levantar la mano bajar aquí y decir que el modelo de e i te be tiene que ser el modelo

por qué se está viendo a évole y el intermedio la agenda informativa no está pivotando en los últimos meses incluso

sobre casos de corrupción que tienen origen del ebro hacia abajo y no

pero evidentemente el modelo nuestro para e i te be no es el modelo de la telebasura ni el modelo telecinco ni el modelo atresmedia y no voy a hablar de la moralidad de los responsables de atresmedia y del presidente de mediaset porque eso daría

convivencia democrática que si lo de lasa y zabala digo y repito el treinta y uno de octubre

un convenio que suple todo eso suple todo eso la convocatoria pública de empleo

somos conscientes de que estamos ante una situación difícil y complicada pero seriamente y dadas las condiciones en las que nos movemos señor unzalu

y además debemos de conseguir estabilizar el empleo público el partido socialista allá por marzo

de la convocatoria pública de empleo era el tema del bilingüismo y si era legal o ilegal yo les pregunto ustedes están de acuerdo con el recurso interpuesto por el señor urquijo dígalo está de acuerdo la defensa del autogobierno que hacen luego es cuando el partido socialista se sube al carro

por qué pegó al balón una patada hacia adelante y pasó las responsabilidades a otros

ustedes y por ustedes e i te be se reduciría a menos de la mitad incluido por supuesto el personal irregularidades no me da mucho tiempo pero vamos a ver en la ope organizada para radio euskadi en otoño del año dos mil nueve pues fíjese

yo simplemente le voy a decir que todas las reclamaciones de la ope actualmente en marcha han sido resueltas negativamente

por unanimidad por parte del tribunal que es a quién corresponde entender sobre esas cuestiones

están los sindicatos repito los sindicatos

y dos personas nombradas por la dirección por lo tanto unanimidad y resueltos todos los problemas la enmienda fíjese ustedes piden un programa de actuación que se reflejen en los contenidos de la programación

señora llanos señora llanos una nueva programación

por el consejo de administración de e i te be en reunión celebrada en donostia el trece de julio del año dos mil trece ahí tienen contenido el programa que presenta y que defiende y que desarrolla y tiene que desarrollar e i te be y su dirección entonces para qué tiene otro programa ahí está uribe etxebarria amaitzen joan amaitu simplemente

diciendo que nuestro reto es saber que e i te be es de todos que es para todos que la tenemos que defender todos y que tenemos que huir

la telebasura política eskerrik asko eskerrik asko

dietela vuestro modelo es

publikoa dena por lo tanto la asignatura pendiente no es con la directora es con el modelo de televisión pública que queremos para este pueblo un debate

sin daros cuenta de que el problema permanecerá mientras no se aborde el verdadero problema que es el del modelo y del funcionamiento eta horri arazo

proposamena egin duen taldearen txanda barrio jauna zurea da hitza muchas gracias señora presidenta señoras y señores parlamentarios
lehendakari y miembros del gobierno yo voy a ser breve porque esta moción

y presentamos precisamente esta moción que quiere servir de impulso al acuerdo en lo que debe ser proteger desarrollar la cultura y el marco estable entre instituciones y sectores culturales y artísticos con proyección al futuro auzolanean es un proyecto de cultura de transición

muchas gracias no es un proyecto que podamos considerar definitivo está planteado para dos años

institucional y sectorial y eso debe dar paso a un escenario estable y sólido de planteamiento cultural en euskadi plural dinámico abierto para los próximos años la interpelación a la señora uriarte era para hablar

del gobierno vasco actualmente el proyecto kultura auzolanean dos mil catorce

y vino presentado como kultura auzolanean como un instrumento para acordar entre agentes públicos y privados la visión estratégica con criterios de actuación y las prioridades para el conjunto de la cultura vasca se hablaba de fases y en la primera fase del proceso

interinstitucionalmente consensuada entre las administraciones vascas en materia cultural para dos mil catorce y dos mil quince

las últimas planificaciones en materia de cultura no han sido las realizadas desde el gobierno vasco en anteriores experiencias y no lo han sido desde luego eso es cierto y ahí están los datos el plan vasco de cultura del gabinete ibarretxe dos mil cuatro dos mil ocho en su momento

esos fines de implantación de arraigo cultural para los que tenían que estar concebidos en relación con su mantenimiento su actuación en el tiempo fueron

está claro que hay que seguir profundizando en apostar por ideas decididas o abiertas para el desarrollo de una política cultural eso sí abierta a todos con todos sin dirigismos ni politizaciones eso está claro y eso creo que debe de ser una hoja de ruta también

lo que son los proyectos culturales en ese sentido son los planteamientos que queremos hacer ya hemos visto

ha tenido unas etapas faltan algunas hemos visto su arranque en julio dos mil trece el documento de comisiones interinstitucional en marzo dos mil catorce

de las aportaciones de las propuestas las reuniones del consejo vasco de la cultura

la valoración de estos proyectos que hemos podido ver

los diez proyectos para dos mil quince los dos bloques de los proyectos por decirlo así

es un buen momento después de este arranque y después de esta andadura para conocer el trabajo y

viéndolo como planteábamos el otro día en la interpelación

interinstitucional ya hemos visto también antes que el consejo de cultura también supervisó vio estudió el programa y dice que para finales del dos mil trece ya se habían puesto en marcha diez proyectos y preparados

también previsiblemente en marcha todavía ya se habló del estado de los proyectos veinte proyectos con tres ámbitos

habrá que enfocar de cara al dos mil quince y para el dos mil dieciséis pero bueno

del observatorio las fabricas de creación políticas fiscales los ámbitos de la cultura análisis de financiación kultur klick

también la promoción de la cultura con una serie de cuestiones que afectan a la danza a la digitalización de derechos a la música a los museos al teatro a las nuevas tecnologías

gran asignatura pendiente en relación con otras cuestiones de patrimonio cultural también digitalización de bibliotecas

y esos dos bloques a caballo entre dos mil catorce y el segundo bloque

y según dice con resultados previstos en dos mil quince bueno pues todo eso habrá que verlo y todo eso habrá que estudiarlo y analizarlo además

de que si hablamos de dos mil dieciséis es una cita cultural de referencia va a ser en euskadi con la capitalidad cultural europea un año relevante y tenemos que ofrecer una cosa clara en materia cultural tenemos que ofrecer una madurez tenemos que ofrecer una expresión cultural una expresión artística

sin dirigismos y encauzada en el diálogo y el acuerdo en castellano y en euskera y que aproveche las potencialidades que son muchas que tenemos los vascos en materia cultural y precisamente llamábamos la atención también en la interpelación

y en algunos grupos de trabajo de algunos representantes institucionales y esa ausencia de colaboración era preocupante sobre todo en el marco

donde vamos a tener los ojos fijados en nuestra capacidad de dirigir de hablar de cultura de proponerla en ese ámbito abierto de la cultura por eso mismo

yo creo que en primer lugar quería ayudar al gobierno a que siga trabajando pero segundo

de cara al futuro de cara a partir del dos mil catorce dos mil quince

a un escenario más sólido y más estable visto lo visto en relación a otros proyectos culturales que no han conseguido afianzarse y afincarse en lo más profundo de nuestras raíces y necesidades culturales por eso mismo instamos al gobierno vasco

en el marco del programa auzolanean busque el máximo nivel de acuerdo lo más importante

instituciones que tienen competencias en materia de cultura y con el sector cultural y artístico vasco con el fin de acometer

un plan de cultura estable sostenido en el esfuerzo de los sectores culturales y de los presupuestos públicos de las instituciones competentes en materia de cultura eso es muy importante preparar

para que a partir de dos mil dieciséis se solidifique un marco de actuación que se sostenga en el tiempo

eso sí amparados por las instituciones no sé lo que los grupos parlamentarios harán efectivamente

del señor reyes en relación con la cuestión la enmienda del señor reyes del grupo socialista luego él lo explicará perfectamente pero yo creo que forma parte

que yo creo que será muy bueno que es positivo desde luego que sí seguir hablando de marcos normativos arraigados

concretándonos en un programa que está en marcha yo creo que lo que tenemos que identificar es que sea lo mejor posible lo que está en marcha que una que sea una partícula que una

y luego yo creo que sí que es cierto que usted plantea un debate de necesidades futuras es decir nosotros hablamos de asentar las necesidades actuales

y en ese sentido yo creo que es un debate interesante el que plantea pero yo creo que forma parte de otro debate menos puntual muchas gracias

egun on berriro guztioi señor barrio me consta

lo que voy a decirle no es una contraposición sino aclarar desde mi perspectiva lo último que usted ha expuesto porque

mi enmienda no pretende mirar al futuro

pero es tan urgente la necesidad de actuación en el mundo de la cultura que el marco que se propone a través de una ley que de una vez ordene el asunto es para ahora urgente mucho más que un plan que es papel y que fiamos además a futuro

lleva el departamento de cultura de este gobierno en qué va a acabar

en su moción habla de acometer con posterioridad al periodo dos mil catorce dos mil quince

poniendo hacia futuro la elaboración de un plan que cuando se acabe ha pasado a la siguiente legislatura

que dé un marco que evite los vaivenes actuales las carencias que tiene la cultura

no es adecuado el que usted presenta hoy la cuestión es que esta legislatura

del departamento de cultura se ha evidenciado la necesidad de definir un marco legal que recoja los derechos mínimos de los ciudadanos en el acceso a la cultura para que nadie pueda quitárselo aunque sea como ahora

la situación es tan mala y eso lo dicen todos los agentes del sector de la cultura que no solo afecta a la supervivencia de esos agentes culturales sino también al derecho de los ciudadanos

la consejera dice que aborda esta situación con el plan auzolanean para el año dos mil catorce y dos mil quince en el que están trabajando ahora que se está acabando dos mil catorce les pongo un ejemplo de que más que aplicar un plan están trabajando durante el periodo que dicen que va a estar en vigor

tiene cuatro líneas transversales este plan primera impulso del observatorio vasco de la cultura pues bien

su impulso hacia atrás dos desarrollo del programa fábricas de creación

con la organización de las fábricas de creación le quitan un setenta por ciento

cuestión vital es cierto propone un análisis de políticas fiscales y análisis y oferta de modelos y vías de financiación este asunto lo lleva a finales del dos mil quince el informe para empezar a actuar en un plan dos mil catorce dos mil quince el asunto de la fiscalidad

el informe para ver qué se hace eso es lo que pone en su cuadro de mando ahora eso sí en dos mil quince quitaron la línea de financiación audiovisual

cuarta línea transversal difusión y hábitos culturales

y el fomento de hábitos y consumo cultural y qué están haciendo en el fomento de hábitos cultural se han cargado el bono cultura que no ha sido sustituido por nada se han cargado kultur klub

en consonancia con el público que es policonsumidor es decir ahora mismo al público hay que darle una oferta cuando se quiere promocionar el consumo cultural que atienda a los distintos sectores actividades actuaciones culturales en vez de esto tarde

inconexa con algunos sectores cuando tenían una herramienta que se podía modificar si se quería dirigida

no hay nada nuevo en lo que se dice que se hace no se está haciendo y lo que se hace es algo de lo que había y eso es así

en kultura auzolanean que es la necesidad imperiosa de incorporar nuevos públicos no está

ni parece que se espere a esa actuación en definitiva tenemos

solo de papel hecho tarde y que no se pondrá en marcha si se acaba de la legislatura cuatro años perdidos en cultura con la que está cayendo y la situación de la cultura no puede esperar por eso los socialistas décimos

al acceso a la cultura ahora así que regule también las obligaciones de las instituciones para garantizar ese derecho

como elemento constituyente de una sociedad democrática y en este sentido presentamos nuestra enmienda y para entender el alcance basta ver que en estos últimos tiempos

su legitimación social su peso un discurso público su protección pública están sufriendo una profunda contracción es curioso que en la constitución

como son los derechos humanos junto con la economía asegura calidad a la vida humana aparece también en el mismo artículo que la libertad la igualdad

y como uno de los principios rectores de la política social y económica se encuentra al mismo nivel que la educación la sanidad la protección social las políticas de medio ambiente las pensiones etcétera

está perdiendo pie en la propia sociedad y no hay ley que la defienda de hecho

no la ha hecho merecedora de texto de ley alguno que le ofrezca un lugar seguro

exceptuando lo relacionado con el patrimonio cultural ni hay tampoco ningún texto legal que garantice los derechos de creadores o de la ciudadanía para su acceso

y hay tiempo para hacer la ley antes de lo que se prevé en la propia moción para hacer un plan de cultura dos años digo que antes que hacer un plan de cultura nosotros proponemos la puesta en marcha

de la cultura en cualquier caso para acabar proponemos una ley de acceso que debería situar a la cultura con sus valores comportamientos y efectos cohesionadores en un espacio troncal del sistema democrático tendría también mejores posibilidades de defensa a los ataques de modelos económicos hostiles y a la vez poder desarrollarse de manera y sostenible también debería contemplar esa futura ley una serie de retos nuevos como la globalización

en este sentido debería ser una ley que reconociera el alcance económico de la actividad cultural su valor en el desarrollo económico para favorecer la unidad de acción y la implantación posterior de programas y medidas concretas transversales con otros departamentos

en la aportación de las políticas públicas a la capacidad de generación económica y de empleo de la cultura y por supuesto a su sostenibilidad y reconocimiento

a las políticas y medidas culturales en el sentido de políticas y medidas centradas en la cultura como tal

producción difusión y distribución de las actividades y los bienes y servicios culturales así como al acceso a ellos cubriría para terminar así

cultural vasca actual que dedica una especial atención a la dimensión patrimonial física de la cultura y menos al desarrollo de sus capacidades artísticas y simbólicas por eso presentamos esta enmienda por eso creemos que es necesario

porque la situación de la cultura no puede esperar y la inacción del gobierno no lo va a arreglar por eso entendiendo la propuesta del señor barrio tengo que decirle que tendré que votar en contra de su enmienda porque

propone y en cualquier caso si sale habremos iniciado una buena andadura y sino saliera anuncio formalmente

el registro de una iniciativa para proponer formalmente

de una nueva ley de acceso a la cultura gracias eskerrik asko reyes jauna

el máximo nivel de acuerdo interinstitucional y con el sector cultural y artístico vasco delakoa hain zuzen eta eh bildun bigarren hanka hori kultura eragileei dagokiena

este gobierno apuesta por las personas y por un país que genera su propia cultura en un permanente diálogo

una apuesta por una sociedad más rica más humana más abierta y más capaz de elaborar su identidad propia en el seno de una identidad europea y con actitud permanente de apertura al mundo

y yo hubiera podido terminar aquí tranquilamente mi intervención pero el señor reyes presenta otro debate mediante una enmienda que no tiene nada que ver con el debate del plan kultura auzolanean y en la que pide una súper ley visto la multitud de cuestiones que plantea abarcar

necesitaría de un importante desarrollo tanto legislativo es decir mediante leyes sectoriales

y dice que el proyecto de dicha ley que no está en el calendario legislativo del gobierno se presente en un plazo de siete meses

y esto lo presenta un grupo que gobernó

mire señor reyes le voy a leer algo que decía el señor arriola cuando era consejero

decía el proyecto de elaboración formal hablando de una ley que tenía entre manos

el proyecto de elaboración formal viene regulado en la ley ocho barra dos mil tres de veintidós de diciembre del parlamento vasco

de veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y tres en este caso se han seguido los trámites reglamentarios exigidos que sin ánimo de abrumar le detallo lógicamente el procedimiento de elaboración de la norma se inicia quédese con la fecha

se redacta el anteproyecto por parte del departamento y se aprueba con carácter previo por orden del diecisiete de enero de dos mil once posteriormente ha continuado su tramitación con multitud de informes e intervenciones

preceptivas que han solicitado a los órganos

a la dirección de normalización lingüística de las administraciones públicas del departamento de cultura emakunde a la agencia vasca de protección de datos al consejo económico y social del país vasco

también se ha solicitado la evaluación previa de impacto en función de género y el informe de control económico

paralelamente a la elaboración y tramitación de estos informes se ha sometido el procedimiento a trámite de audiencia de los ciudadanos y ciudadanas y se ha sometido a participación

con revisión del texto de proyecto así como audiencia a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a ciudadanos afectados

consta en el expediente que se han realizado más de noventa notificaciones entre otros a sindicatos asociaciones de promotores y consultores

colegios profesionales entidades bancarias asociaciones de vecinos partidos políticos etcétera muchos de los cuales han presentado alegaciones

como interior empleo y asuntos sociales economía y hacienda medioambiente política territorial agricultura y pesca

sanidad y consumo justicia administración pública cultura a presidencia del gobierno así como al consejo municipal vasco

el correspondiente informe de memoria sobre las alegaciones presentadas y se ha notificado una respuesta expresa a las entidades que la han formulado con posterioridad se han realizado los informes legales correspondientes el informe a memoria económica

en julio de dos mil once es decir siete meses después del inicio el informe de la oficina de control económico de doce de marzo de dos mil doce es decir casi quince meses después del inicio y

a esta cámara y dice también la verdad es que la tramitación de un proyecto de ley tal y como está articulado el procedimiento y legalmente

y dice el proyecto de ley como le digo tiene una tramitación muy ardua que venimos desarrollando que iniciamos en enero del año pasado y nos ha traído hasta aquí esto lo dice

de dos mil doce es decir dieciséis meses después y como saben este proyecto de ley que estaba en el calendario y que ya tenía perfectamente delimitados todos los ámbitos se presenta el quince de junio de dos mil doce a prisa y corriendo por todo ello este están ustedes pidiendo que se hagan una ley en siete meses una ley marco

sin definir para nada hay que empezar hacer

hay que delimitar los ámbitos antes de empezar el anteproyecto

por lo tanto el argumento que dice que esta ley es para resolver problemas urgentes que hay a día de hoy

cuando hace esta afirmación para justificar hoy en el sentido de que tiene que ser para resolver los problemas ahora esta ley que usted plantea no puede ser como tal a parte que no resolvería ninguno de los problemas

en un plazo de siete meses no se puede traer es absolutamente imposible

al menos lo dicen cuando gobiernan por lo tanto señor reyes

es que el programa auzolanean está en marcha está en marcha

gipuzkoa le dieron ese visto bueno ayuntamientos están trabajando en las comisiones grupos de trabajo el sector es que se está trabajando efectivamente sin mucha visibilidad es cierto pero vamos a ver si

ya le decíamos que estos años en materia cultural es una época de recortes efectivamente lo estamos viendo trataremos de compensar de alguna manera en el debate presupuestario pero lo que hay que hacer es

es muy importante nosotros no queríamos perder más el tiempo y darle un impulso desde el parlamento por eso pretendemos dos cosas primero llamar la atención como lo tratamos de hacer con la interpelación

para que sea ese futuro plan de cultura

esa política cultural futura y desde luego también fomentar el acuerdo

con el sector señor reyes yo vuelvo a decir que es buena su idea es buena yo además es que me gusta la idea en relación con un planteamiento de futuro un proyecto de ley de acceso a la cultura de cultura pero eso es muy ambicioso señor reyes es muy poco es un plazo cortísimo para eso sí un buen texto normativo con todos los condicionamientos que tiene usted lo sabe

información pública y sobre todo el fondo

el fondo del asunto de lo que se va en un acuerdo además

un acuerdo con muchos sectores culturales y artísticos que son muy variopintos que son heterogéneos por no decir también con la universidad con los productores

y además luego es la tramitación parlamentaria después o sea que en una ley que tendría que ser muy importante y que no figura además en las previsiones es decir yo sí que entiendo y que es bueno ese debate y lo haremos además si lo va a traer usted lo ha anunciado algo acordaremos yo creo que importante de cara al futuro y que marque de referencia pero nosotros necesitamos presentarnos en dos mil dieciséis año capitalidad cultural europea es decir que todavía parece que no nos lo creemos del todo que es un año muy importante necesitamos presentarnos en dos mil dieciséis con algo y señor reyes lamentablemente para una ley no hay tiempo y nosotros en ese sentido qué es lo que preferimos lo que preferimos es seguir de cerca el proyecto cultural del gobierno que además

están implicadas otras instituciones y trabajando otras instituciones y desde luego

controlar al gobierno impulsar si hace falta y entender cuál es la acción que pretende el gobierno para años siguientes vuelvo a decir

no han funcionado ni el plan de la época del señor ibarretxe ni el plan lamentablemente del señor lópez vamos a tratar siguiendo de cerca

elementos culturales que funcionen muchas gracias eskerrik asko barrio jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den reyes jaunak dauka hitza

que cuando está de acuerdo en que se haga la ley y está de acuerdo en que es necesario

dice bien poco a favor de ese acuerdo pero en fin bueno señor

tiene usted una virtud como parlamentario que es emponzoñar

es busca siempre alguna frase para lograr que tenga el parlamentario que tener alguna reacción destemplada dice usted que falto a la verdad cuando presento esto pero por qué usted dice eso por qué me falta al respeto

cuando presentó una enmienda podrá decir que no está de acuerdo sí lo ha dicho falta a la verdad es decir por qué dice usted que yo falto a la verdad cuando presento una enmienda oiga eso yo lo podría decir a cualquiera de ustedes cada vez que presenta una enmienda pero cómo se atreve

sí sí es que siempre es que ya está bien no se puede tener un debate sereno con usted mire

la altura la altura que le da usted la altura política la consideración política

ha quedado clara con su intervención disponía de casi ocho minutos para hablar sobre mi enmienda que es a lo que se ha dedicado y ha dedicado usted a una cuestión de procedimiento a leer el procedimiento para hacer un proyecto de ley a ver cómo estaba oiga es que lo importante es si son seis meses o un año le doy el año si me da igual le doy el año me da igual

cuando yo he dicho que el departamento de cultura está inactivo y va tres años cuando la gente de la cultura está desesperada claro es que usted aquí sí habla de cultura pero usted no habla con la gente de la cultura porque sino quien miente es usted

nacionalistas y no nacionalistas están desesperados con este gobierno y eso es así

por cuestión de trato o de no trato de no consideración de hablar y no hacer

y la cultura no aguanta más porque la crisis sobre un sector débil hace más daño y un tejido que se hace en gran medida atomizado con gran voluntarismo personal cuando se destruye cuesta mucho construirlo por eso le digo que a usted

pero a usted no le importa la cultura cuando habla de cultura la sutileza la sensibilidad está fuera de su

las utiliza pero cuando sale aquí a hablar de cultura nunca habla de usted de cultura y no siente nada por la cultura no entiende lo qué pasa con la cultura

lo que está pasando en la calle con la cultura es así y cuando estamos diciendo que tiene que venir urgentemente un proyecto de ley que hable del acceso a la cultura estamos hablando de una necesidad perentoria porque planes de papel ya no sirven

que usted está diciendo que el pnv siga sin hacer nada dos años porque no está haciendo nada con auzolanean y luego es lo que dice su moción

con lo que usted ha expresado son cuatro años más y la cultura qué vaya usted y cuénteselo

o actuaciones culturales con la distribución comercial de la cultura vaya y cuéntelo por favor dice usted una superley vuelvo a repetir no tiene usted ninguna consideración por la cultura es una superley la ley de educación la ley de sanidad son superleyes

la educación es importante pero la cultura no porque cuando para alguien algo es muy importante y además

dice voy a ver cómo lo puedo hacer no dice es una superley y además en el tiempo de ustedes no se hace pues entonces no lo hacemos oiga no

pero diga cómo la va a hacer y cuándo diga eso que estamos hablando de cultura

no estamos aquí un juego de farfulleo entre políticos que voy a decir que son de otra época para no decir

señor reyes tiene un serio problema de comprensión yo no me he referido a la falsedad al mero hecho de la presentación de la proposición si no lo que haya dicho usted en el sentido de que esta proposición

cuando resulta que esta proponiendo hacer una ley que como mínimo nos va a llevar un par de años mínimo mínimo

no voy a entrar ahí sí es cierto que tengo la sensación

por no sé qué agravios la primera y también esta pero bueno

mire si tan importante era para usted esta ley si tan importante son los contenidos que usted plantea oiga por qué no la presentaron ustedes

pero si tan claro lo tiene si tiene tan bien definido los ámbitos qué ha estado esperando qué ha estado esperando

kultura auzolanean para hacer la proposición hombre un poquito más de seriedad que no

mire usted en cuanto al contenido

como mínimo hay que analizar

el ámbito de aplicación en los ámbitos competenciales la legislación básica la propia estructura del ámbito regular todo esto estaría por hacer antes de comenzar

el anteproyecto y usted lo sabe y usted lo sabe por no entrar ya

si no sabe lo que es una ley marco por lo menos no diga lo que ha dicho primero aprenda lo que es una ley marco y luego dice lo que tenga que decir

señor reyes ustedes le piden al gobierno que se toque la espalda con la rodilla yo le podría decir que me lo justifique haciendo el pino pero lógicamente esto sería un circo

al respeto a este parlamento qué es lo que ha hecho usted hoy aquí con la propuesta que ha hecho está haciendo una propuesta que sabe que es imposible de ejecutar

una ley semejante a este parlamento lo sabe de sobra por lo tanto mire yo les pediría que reconsideren lo que están planteando

si no es por respeto a esta cámara por la credibilidad que tiene que tener porque propuestas de estas señor reyes no aportan absolutamente nada breñas andreari